su educación su protección social por encima de todo lo demás

la seguridad de nuestros pueblos con las y los mejores consejeros a la cabeza estas son las claves del modelo euskadi

iñaki azkuna como consejero de sanidad hizo posible con su vocación de servicio público trabajo esfuerzo y dedicación plena

con la persona como eje de su acción que continúe situando a euskadi al nivel de los países europeos con una distribución de renta más

que analiza la desigualdad en la distribución de la renta en euskadi nos sitúa al nivel de los países igualitarios en el contexto europeo comparando el índice de gini de la ue quince solo suecia obtiene un mejor resultado somos

donde la diferencia entre quienes más tienen y quienes menos tienen es menor euskadi es un país más igualitario por ejemplo que finlandia

que alemania que francia y en eaj pnv queremos que siga siendo así que soportemos y superemos la crisis sin caer en la temida e injusta desigualdad azken asteotan

goian bego iñaki azkuna secretario general de la presidencia del gobierno vasco

alcalde de bilbao un recuerdo emocionado en nombre del pueblo vasco persona comprometida responsable público cercano

reciba hoy nuestro recuerdo y homenaje el de todas y todos iñaki azkuna

reitero señora gorospe que dos mil trece y dos mil catorce van a ser dos años difíciles ha sido

estamos teniendo que proceder a una dura consolidación fiscal hemos primado la orientación social del presupuesto seguimos empeñados en el máximo rigor es la garantía del mantenimiento del estado social del bienestar

hemos concertado medidas en el ámbito del estímulo y apoyo a la economía real la orientación por la que usted me pregunta es favorecer el empleo como elemento de integración

helburu horretarako izango dira la prioridad de nuestro modelo es la atención a las personas a las que usted hacía referencia en su pregunta

y universales cuando vemos que en el entorno se debilitan estos servicios somos conscientes de que mantenerlos demanda un esfuerzo colectivo no hay dinero para todo sí lo va a haber para salud educación y protección social esta es la base del compromiso social y quiero hacer un reconocimiento expreso a la sociedad que está entendiendo las medidas del gobierno en un escenario de dificultades presupuestarias hau da gure oinarria

benetako ekonomia laguntzen jarraitzeko sobre la base del compromiso social construimos el crecimiento sostenible en un mes

el programa de internacionalización para favorecer la apertura al mercado exterior el nuevo consejo vasco de ciencia tecnología e innovación
internacionalización e innovación son las herramientas del modelo vasco de desarrollo económico eskerrik asko eskerrik asko

beraz hori da nik neuk neronek pentsatzen dudana señor isasi usted y yo vivimos en el mismo mundo real

instituciones financieras liquidar obras sociales e invertir sumas millónarias en recursos bancarios en rescates bancarios en el mundo real en el que también

y entidades incluidas desde el año dos mil once hasta hoy podríamos poner también muchos ejemplos en ese mundo real kutxabank es una institución que merece todo nuestro respeto primero ha procedido a una integración de las tres cajas vascas que sin ayudas ha resultado exitosa hoy es un buen día creo que para reconocerlo segundo ha mantenido y cumplido su compromiso con la obra social y tercero

el compromiso demostrado con el arraigo la obra social y la transparencia son para nosotros y para mí en particular la mejor garantía del futuro y seguiremos trabajando para que así siga siendo en kutxabank eskerrik asko

cuestión de los mercados insisto en lo que ha supuesto lo que es ajustarse a los marcos regulatorios que afectan a todas las instituciones

incluidas también las cooperativas de crédito y creo que es esto lo que necesitamos reconocer en cuanto a lo que es vivir en un mundo real yo

lo han conseguido las instituciones fundadoras los impositores los trabajadores que forman parte de los consejos

le expreso la solidaridad de los socialistas con su partido

más allegadas al señor azkuna lehendakari hace unos días usted

el enfrentamiento permanente en la política en el forum deusto hizo una

que a mí me preocuparon enormemente y esto es el objeto de esta pregunta porque hacía

una expresión durísima cuando decía que en este parlamento se extreman las posturas de oposición

se utiliza la vida parlamentaria como ariete de desgaste político y del gobierno se tensan los posicionamientos socioeconómicos se extreman posturas críticas

y por otro lado que no tenían un soporte un apoyo

que me ha parecido oportuno hacerle esta pregunta no quiero prejuzgar por qué dijo esto lo que quiero es saber en qué actividades parlamentarias se residen

leyó toda la conferencia señor prieto la conferencia que yo ofrecí en la universidad de deusto en todo caso la conferencia y quiero situarlo en ese contexto el párrafo al que usted hace alusión

parlamentario del grupo socialista también en el pleno ordinario de la semana pasada

de responsabilidad de solidaridad y apuesta por el compromiso público y la dignificación de la política esto es lo que yo quiero subrayar

a ese párrafo y con esa intención afirmo que en el camino del acuerdo en torno a los grandes consensos de país hemos avanzado mucho y tenemos mucho que avanzar

ante el temor que se refleja de lo qué es su pregunta desprende también que es evidente que seguimos teniendo mucho que avanzar las frases o el párrafo que usted me espeta

atrás y me refiero no ya a la estrategia que en el parlamento los grupos parlamentarios de la oposición puedan tener para con el gobierno no no sino a la estrategia

de relaciones entre las formaciones políticas entre todas las formaciones políticas y su plasmación pública entre lo que puedan ser acuerdos de fondo a acuerdos que se puedan generar entre los diversos grupos parlamentarios y luego las criticas que se hacen también coyunturales

de la política en el parlamento vasco así le voy a leer lo que dije soy consciente de las dificultades y las asumo creo en la capacidad transformadora de la acción política siento la necesidad de una convivencia normalizada que contribuya a prestigiar la iniciativa pública

yo insisto en que hemos alcanzado importantes acuerdos que prestigian la acción política el programa marco para el empleo y la reactivación para tres años la estabilidad presupuestaria

esa expresión con alguna precisión complementaria pero le voy a explicar por qué a mi juicio son unas declaraciones muy duras y además en un espacio yo creo muy equivocado usted va a la universidad de deusto usted va a un foro donde

en términos muy amplios preside ese espacio y yo creo que sitio ideal todos lo son pero ese especialmente para prestigiar la política para que usted prestigie la política para que usted trate de demostrar cuáles son los avances usted tiene una responsabilidad política que excede de lo que es su persona

usted es lehendakari es la máxima representación política de todos los vascos y por lo tanto tiene que ejercer como tal y muchas veces tiene que estar al margen

para que haga estas afirmaciones de que aquí hay unos enfrentamientos tremendos porque este es un parlamento donde usted tiene un tercio de los apoyos y sin embargo es lehendakari es lehendakari del país vasco con un tercio de los apoyos este es un parlamento donde a usted le ha dado presupuestos con el concurso del partido socialista pero le ha dado presupuestos

y sin embargo está usted en una posición política de minoría por lo tanto este es un parlamento que como se ve

y que hace política de manera muy constructiva y por lo tanto prestigiar la política no es hacer afirmaciones

usted ha hecho sino es todo lo contrario es tratar de demostrar la utilidad de este parlamento

mire ha habido muchos episodios que usted como responsable político los ha protagonizado y quizás

no tuviera la eficacia correspondiente durante un año estuvimos aquí

lo hizo de una forma fallida lo ha hecho exactamente igual con otras políticas con las políticas del diálogo social con las políticas del empleo en fin usted ha tomado iniciativas muy particulares que se han estrellado contra lo que podía ser una mayoría en esta cámara usted no ha tenido una sensibilidad especial en buena parte de su mandato con estos aspectos sin embargo en este parlamento se han corregido y se han podido sacar políticas adelante por lo tanto estaría bien que

de forma más positiva a este parlamento eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor prieto reitero no sé si usted se ha leído la conferencia
y veo que en la segunda intervención demuestra que no se la ha leído ni sabe contextualizar la conferencia que yo ofrecí

sé perfectamente lo que dije tanto en la conferencia en la disertación como en las respuestas a las preguntas le animo a que recurra usted otra vez a lo que es la conferencia y a lo que fueron las respuestas

si aludimos a unos determinados valores ser coherentes con esos valores también en el ejercicio de la política y no se preocupe usted por mí molesta más o me deja de molestar el hecho de que se me critique sé perfectamente cuál es el papel que me corresponde y creo que no demuestro cuando lo que son las criticas razonadas

mire compartimos una nueva oportunidad y usted ha hecho referencia también a los acuerdos a los que yo he hecho referencia y que subrayo en todo momento que tengo oportunidad para ello

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari en nombre del grupo popular y del partido popular del país vasco traslade nuestro pesame a la familia del señor azkuna y desde luego la solidaridad a sus compañeros y amigos del partido nacionalista vasco y

tenemos que decir que el mes de febrero pasado no ha sido un buen mes para euskadi en términos económicos o en términos de empleo o de paro

vamos rezagados en la creación de empleo respecto al resto de españa lo mismo cabe decir en cuanto a afiliados a la seguridad social

respecto al resto de españa en lo que es la creación de empresas y es evidente que la creación de empresas

nuestra pregunta y nuestra preocupación para traer este asunto

y nos preocupa mucho porque teóricamente nosotros somos una región un país que vendemos que cuando en nuestro entorno va bien nosotros tendríamos que salir los primeros o ir mejor y sin embargo estamos viendo que eso no está ocurriendo en este caso cosa que sí ha ocurrido otras veces y por eso la preocupación que tiene mi grupo

poco a poco pero antes se decrecía de que el paro va descendiendo poco a poco pero antes se incrementaba nosotros parece que no nos estamos enganchando a ese movimiento que está ocurriendo en el resto de españa no es nuevo que estemos a la cola de españa en la creación de empresas por eso hace

este grupo planteó y se aprobó prácticamente por unanimidad en esta cámara la ley de apoyo a los emprendedores ley que sigue sin desarrollarse y por eso nosotros tenemos la pregunta que le hemos hecho ya sabemos que han remitido el plan pero nuestra pregunta es cuándo

la creación de empleo y el desarrollo de la ley de emprendedores eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

y el mantenimiento de la actividad emprendedora y de cualquier otra característica que nos permita desarrollarnos económicamente para mantenernos también a la cabeza de un país con un desarrollo humano sostenible eso usted lo conoce sin embargo aunque es cierto que el índice tea el total entrepreneurial activity de euskadi sigue por debajo de la media estatal debido

a lo largo de los años dos mil nueve y dos mil diez la tendencia empieza a ser positiva y no es en absoluto cierto que el país vacó esté a la cola de españa y le voy a dar unos datos porque a usted

las afirmaciones según datos del instituto nacional de estadística conocidos en dos mil catorce

en euskadi se crearon trescientos cincuenta nuevas empresas lo que supone un catorce coma cuatro por ciento más que en enero de dos mil trece y eso supone que en euskadi se ha incrementado

número de empresas el porcentaje interanual ha sido el segundo después de la rioja por encima por supuesto de la media del estado que ha sido un uno coma uno por ciento casi plano mas datos según el eustat en diciembre de dos mil trece se constituyeron trescientos cinco empresas

y se disolvieron únicamente veintiocho coma siete es decir la media del estado en crecimiento fue un diez coma nueve la nuestra un treinta y dos decrecimiento el nuestro mucho menos que en el estado también más

en la seguridad social en la comunidad autónoma en febrero de dos mil catorce fue de ochenta y seis el mejor dato desde el año dos mil ocho en cualquier febrero desde dos mil ocho si atendemos a datos globales de dos mil trece la creación de empresas en euskadi aumentó un seis coma siete por ciento mientras que se disolvieron

es cierto que en otras comunidades crecieron más se crearon más empresas pero también se destruyeron más empresas y lo importante estaremos de acuerdo no es tanto en cuanto se crean sino cuántas se mantienen cuánto empleo se mantiene y en definitiva empleo estable mantenemos la diferencia en euskadi ha sido mejor que en el resto del estado también ha sido además en euskadi en dos mil trece la comunidad que mayor número de sociedades ha constituido en cuanto a capital o en el que el capital medio mejor dicho suscrito en cada empresa ha sido mayor de ciento ocho mil euros frente a setenta y dos mil en el resto del estado por tanto no es cierto esos datos que usted nos estaba dando

sigue desarrollando como usted bien conoce la ley de emprendedores que sin duda tendremos ocasión de continuar en el segundo turno eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

señora consejera a ver si le suena este dato en el último año hemos perdido novecientos dos empresas hasta la fecha no sé si usted está

contenta o encantada de cómo vamos le repito vamos a la cola de españa en la creación de empleo vamos a la cola de españa en afiliados a la seguridad social

pero que concuerda con los meses anteriores y la pregunta que yo le he hecho que es muy concreta es cuándo piensa este gobierno porque nosotros seguimos a la cola de españa en la creación de empresas y sobre todo de empresas que crean empleo porque no es lo mismo crear cien empresas con un empleo a que cierre fagor y se vayan a la calle quinientos personas a lo mejor le sale a usted un saldo muy bueno pero el saldo para los ciudadanos es muy malo

mi pregunta era muy fácil y muy concreta mi pregunta es si la prioridad de este gobierno es esa que usted dice yo

pero cuándo vamos a ver las medidas concretas que en esa ley se esperaba que estuvieran ya en vigor y que no están las va a poner en marcha este gobierno me refiero a la ventanilla única a la capitalización del desempleo a la compensación de tasas municipales a la creación de fondo del capital semilla que tenía que desarrollarse mediante un decreto
hace dos años a los microcréditos o al directorio que este gobierno tenía que crear eskerrik asko damborenea jauna jaurlaritzaren ordezkariak tapia anderea zurea da hitza

encantada no señor damborenea pero lo datos son los datos y las creencias las creencias usted cree yo le he dado datos estamos desarrollando la ley

en marcha artículo doce mesa interdepartamental en marcha apoyo al emprendimiento de proyectos de carácter innovador artículos catorce y quince de la ley también existen diversos no se los voy a leer todos fondo de capital riesgo artículo diecinueve también dotado con cinco millónes de euros directorio vasco de redes de inversores privados

por tanto señor damborenea estamos cumpliendo la ley y estamos cumpliéndola de forma bastante ágil por otra parte y usted lo conoce bien eskerrik asko eskerrik asko

de upyd con usted con los familiares con los allegados con los compañeros de partido de iñaki azkuna gran alcalde y extraordinaria

o al menos intentar ser al menos durante cierto tiempo por lo tanto mi homenaje también para él descanse

las personas allegadas le pregunto señor lehendakari por la corrupción en euskadi le pregunto si le preocupa la corrupción

en euskadi y le pregunto muy directamente cuáles son las medidas que en los últimos tiempos el gobierno vasco ha puesto en marcha para luchar más y mejor contra la corrupción

en marcha en el futuro inmediato para acabar con esta lacra gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko gobernuaren

señor maneiro vaya por delante el agradecimiento del gobierno y en nombre del lehendakari por sus condolencias con respecto a la pregunta se lo puedo decir con absoluta claridad la lucha

prioritarios de este gobierno por el que todos sus componentes estamos trabajando con la máxima contundencia claridad y determinación usted cita en la interpelación no lo ha hecho aquí pero supongo que es su punto de referencia fundamental memoria de la fiscalía la última le recuerdo en primer lugar que la memoria de la fiscalía

hace referencia al dos mil doce y que este gobierno se constituyó el diecisiete de diciembre del dos mil doce por tanto todo lo que dice la memoria para bien y para mal que también aplaude algunas cosas se puede referir a otras instituciones o a otros gobiernos pero en ningún caso al gobierno presidido por el lehendakari urkullu en segundo lugar

la mayoría de las cuales poco tienen que ver con el ámbito competencial de la comunidad autónoma se plantean reformas legislativas la ley orgánica del poder judicial

las cortes generales se plantea una mayor dotación de la fiscalía con fiscales anticorrupción algo que solo pueden decidir las instituciones centrales del estado y sí se plantean otras cuestiones como por ejemplo una mejor actuación una corrección de lagunas prácticas judiciales

de este gobierno o incluso de este parlamento pero en lo que sí concierne a la labor del gobierno del que tengo el honor de formar parte le puedo decir que todas las cuestiones que se plantean han sido escrupulosamente estudiadas

aspectos más relevantes en lo que tiene que ver con el acceso automático a las bases de datos que lo pedían

el acceso automatizado a todas las bases de datos de carácter económico comercial y mercantil que existen en el mercado por tanto

solicitaban poder participar en los cursos de formación que se imparte en ivap una puerta que está absoluta y radicalmente abierta por supuesto

del cargo que ocupo y en relación con los medios informáticos le puedo asegurar que el gobierno está haciendo todo lo que puede para dotarles de medio informáticos

la complicidad por tanto del gobierno con la lucha contra la corrupción que acometen que llevan a cabo los fiscales de la comunidad autónoma es total muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna

una serie de medidas que debería tomar tanto el gobierno vasco como el gobierno de españa es decir es una memoria

se dice básicamente que en euskadi y no digamos ya en el resto de españa no se hace ni de lejos todo lo posible para luchar contra la corrupción y plantea una serie de medidas que se las exige al gobierno de españa y otras al gobierno vasco ustedes suelen pedir habitualmente más competencias al gobierno de españa pueden también plantear pedir al gobierno de españa más medios por ejemplo para luchar contra la corrupción y no lo hacen y en todo caso a día de hoy tanto los medios materiales como los medios humanos son claramente

hay determinados casos de corrupción en euskadi que parecen absolutamente atascados caso zubiaurre del partido nacionalista vasco va para cuatro años caso legarreta ex alcalde de bermeo casi tres años caso

partido nacionalista vasco desde el dos mil diez caso

van más de cinco años caso margüello caso épsilon caso de miguel ex número dos del partido nacionalista vasco en álava cuenta ya con veinticinco imputados en este caso concreto la ertzaintza tardó más de un año

que habitualmente se suele entregar en menos de tres meses es decir

que hay casos que están atascados y que se alargan en el tiempo sin que se resuelvan y yo creo que el gobierno vasco ahí tendría mucho que decir y también el gobierno de españa el fiscal superior del país vasco hace unos días decía la tardanza es injustificable desmoraliza el tribunal superior de justicia acaba de solicitar de apoyo una medida interesante podría ser por ejemplo la implantación de una fiscalía anticorrupción en euskadi que depende efectivamente del gobierno de españa pídanla ustedes

y el resto de grupos no lo apoyó o alguno de los grupos no lo apoyó reivindiquen ello para luchar más y mejor contra la corrupción por lo tanto menos exigir más competencias y más facilitar más medios contra la corrupción

más medios humanos más voluntad política es una lacra absolutamente inaceptable y creo que el gobierno vasco debería

los datos y algunos otros datos que no he podido dar durante

señor maneiro yo comprendo que usted que es único en su grupo parlamentario tenga que acogerse con frecuencia al método de cortar y pegar recortes de periódicos para formular sus iniciativas porque su interpelación es literal de

pero solo le pido un poco de rigor mire en lo que respecta al gobierno central

pedir lo que usted quiera pero el gobierno central es el competente en tomar una serie de decisiones que este gobierno no puede pretender

y en lo que se refiere a las decisiones de este gobierno le he dicho con claridad que hemos atendido a todas las que se plantean en la memoria de la fiscalía a todas las que se

se le ha olvidado decir una cosa de la comparecencia del fiscal superior del país vasco a instancias suyas que le preguntó varias veces por activa y por pasiva respondió literalmente el gobierno vasco

y este es un tema de principio esto se lo a dijo usted por mucho que quiso

señor lehendakari usted durante su intervención en la conferencia que pronunció en el forum deusto sobre la idea de euskadi dos mil veinte aseguró

euskadi contará con un nuevo estatus político acordado y refrendado por la ciudadanía vasca desconocemos el alcance real de su propuesta respecto al nuevo estatus

el actual marco que nos da el estatuto de autonomía de un gran abanico competencial nos hace sospechar sobre sus verdaderas intenciones

a la retórica vehemente de alguno de sus predecesores tratará de desbordar el actual marco jurídico desde este partido apostamos por marcos políticos que ofrezcan certezas

las incertidumbres no son buenas consejeras señor lehendakari y si queremos crecer tenemos que crear espacios de convivencia donde la certidumbre sea una de nuestras principales señas de identidad y si todos necesitamos certidumbre aún más lo necesitan las personas mayores su propuesta de nuevo estatus

en aspecto como la convivencia pero también en la economía

de que nuestro sistema de seguridad social es claramente deficitario este hecho conlleva a que el sistema de pensiones en euskadi presente un déficit acumulado en los últimos años que si no fuera por la solidaridad interterritorial sería inasumible para las arcas públicas vascas en los términos actuales por tanto ante sus declaraciones sobre su propuesta de nuevo estatus político y las incertidumbres que ello plantea queremos conocer señor lehendakari cómo piensa garantizar en el futuro

en todo caso y antes de responder a la pregunta en cuanto a lo que como lehendakari planteo en una conferencia y cómo pienso garantizar en una futura nación vasca el poder adquisitivo actual de las pensiones en el país vasco antes de llegar a ese futuro permítame señora llanos permítame usted un comentario del pasado y del presente al que también usted ha hecho referencia porque le recuerdo le recuerdo señora llanos que usted ha hecho mención al marco y ha hecho referencia también al estatuto de gernika y le recuerdo que el estatuto de gernika asigna a euskadi

esta es una ley que el gobierno español no cumple señora llanos y esto es presente señora llanos por qué no nos dedicamos también al presente le voy a recordar también lo que el gobierno español del partido popular ha hecho con las pensiones en dos años y medio

lo primero fue incumplir su programa electoral suspendió la revalorización de las pensiones que se regulaba por ley inventó un nuevo cálculo que ha actualizado las pensiones

que ha perdido una quinta parte de sus recursos su partido señora llanos acumula dos incumplimiento de ley y una reducción del fondo de reserva y ahora sí

estas cotizaciones las aporta también la población ocupada y la población ocupada en euskadi es diez puntos superior a la ocupada en españa señora llanos en conclusión la garantía de las pensiones aquí es por lo menos diez puntos superior este es el futuro de las pensiones mejor en euskadi que

señor lehendakari usted hablaba antes de creencias y de que lo importante eran los datos la realidad en este apartado es incuestionable y los datos no engañan las previsiones demográficas para el futuro de euskadi no son precisamente halagüeñas en la actualidad tenemos

lo que supone un veinte por ciento pero es que es más para el dos mil veinte ese porcentaje habrá aumentado en un diez por ciento y para el dos mil veintiséis en un veintidós por ciento

la población entre dieciséis y sesenta y cuatro años decrecerá un once por ciento y así si en el año dos mil diez por poner un ejemplo había tres coma cinco personas

solo habrá dos coma dos y ello supone que la tasa de dependencia económica va a pasar de un veintiocho por ciento a un cuarenta y cuatro por ciento y según las previsiones del eustat en el año dos mil cincuenta será del sesenta por ciento esos son los datos y eso es el futuro porque el presente será importante señor lehendakari pero el futuro lo es aún más y para los pensionistas

tenemos que añadir además que en euskadi tenemos las pensiones más altas de toda españa y que las tasas de natalidad son las más bajas de todo el país por lo tanto se pongan como se pongan la ecuación

decrecimientos de flujos migratorios y escasa natalidad que ponen a las claras que las pensiones de los vascos solo tienen futuro señor lehendakari dentro del sistema actual de caja única y usted quiere hablar de presente pues hablando de presente acumulamos desde el año dos mil cinco

nuestros pensionistas en este momento no podrían cobrarlas no las tendrían garantizadas por ello

en clave de país y tenga en cuenta que este país solo tiene futuro si formamos parte del proyecto común

y verá que el futuro de euskadi el de las pensiones también pasa ineludiblemente por la unión la cohesión

mire señora llanos usted pone en duda nuestra capacidad para gestionar las pensiones pone en duda la capacidad de gestionar las pensiones sí señora llanos y lo hace ni más ni menos tomando que como referencia a españa y dentro de lo que es una referencia de lo que son los datos en el conjunto del estado español y

cuando son previsiones a futuro las previsiones no son datos las previsiones son previsiones y yo me quiero referir a los datos me he referido antes al dato del estatuto de autonomía de gernika que está por cumplir y eso es pasado y eso es presente

en españa insisto el paro es diez puntos mayor que en euskadi el déficit público es cinco puntos mayor y el endeudamiento sobre el pib es ochenta puntos mayor

del de euskadi y en lugar de contribuir a que se cumpla la ley a que gestionemos desde aquí las pensiones de una forma más eficaz viene usted aquí a plantear el antimodelo

unos datos pero oculta por ejemplo que euskadi también contribuye al fondo de reserva aplique usted señora llanos el seis coma veinticuatro y verá que nos corresponden

y la sociedad vasca sabe que gestionar las pensiones en euskadi

sí gracias el gobierno ha anunciado que va a comenzar a elaborar un informe que revise y cuantifique el número de atentados sin esclarecer de

entre los que incluye a eta al parecer los objetivos de este trabajo que finalizaría en otoño es por un lado analizar si las víctimas de dichas acciones violentas reciben el tratamiento a que tienen derecho según los estándares de naciones unidas y por otro lado

que puedan ser beneficiarias de las políticas de reparación según se dice del gobierno vasco el informe al parecer será elaborado por un grupo de tres personas es un informe con un presupuesto de

euros lo cierto es que el esclarecimiento de los atentados sin autor conocido de eta es una de las principales

y también de upyd un partido político que en los últimos tiempos en los últimos años ha planteado esta cuestión en varias ocasiones en sede parlamentaria

desde luego no el apoyo del grupo de los nacionalistas vascos sino más bien

y que el gobierno pues prácticamente no podía hacer nada para ayudar a esclarecer los

se nos decía que no presentáramos este tipo de iniciativas se nos decía que buscábamos la confrontación

en este parlamento ustedes ahora plantean informe y se comprometen a realizar esos trabajos que ustedes han planteado y han dicho ante la opinión pública la pregunta es clara qué medidas pretende ahora el gobierno vasco impulsar para esclarecer los atentados cometidos por eta que a día de hoy se encuentran sin esclarecer

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro empezando por el final

cumple con compromisos con sus compromisos y es además transparente

el primero de los tres compromisos del plan de paz y convivencia es la clarificación del pasado el primero no se puede construir el futuro como si nada hubiera ocurrido en el pasado

sobre la violencia y la vulneración de derechos humanos para hacer efectivos los principios de verdad justicia y reparación y quiero insistir la iniciativa

que presentamos en junio del año pasado y antes de esa fecha también ya habíamos trabajado la iniciativa uno del plan persigue ese objetivo en junio se presentó el informe de constatación de vulneraciones de derechos humanos

de constatación de vulneraciones de derechos humanos mil novecientos sesenta dos mil trece este informe recomendaba actuaciones para la clarificación de atentados y violaciones de derechos humanos no esclarecidos este es el objetivo del estudio ahora encargado

conocer para actuar y esta es una materia que requiere una clarificación señor maneiro corroboro con usted la necesidad de abordar esta cuestión le pongo un ejemplo usted en su pregunta dice que hay trescientos asesinatos de eta sin aclarar la semana pasada covite

sí gracias señor lehendakari yo en la pregunta que le planteo hablo de más de trescientos

hay algún estudio interesante que alguna asociación de víctimas ha realizado en los últimos tiempos un gran trabajo han realizado

este gobierno y el partido nacionalista vasco durante largos años se ha caracterizado por la inacción sí señor lehendakari inacción absoluta en relación

pendientes de resolución un tercio de los atentados cometidos por eta están pendientes de resolverse

que un tercio y el partido nacionalista vasco en el pasado y en relación a esta cuestión no ha hecho absolutamente nada a pesar de que este grupo ha tratado

aquí siempre se nos decía que no había nada que hacer o que lo que se estaba haciendo ya era suficiente no se le ocurre a usted ninguna medida concreta para aclarar estos crímenes exigir a los presos de eta el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario romper con la banda pedir perdón

el más importante para este asunto colaborar con la justicia es decir exigir a los presos de eta cosa que el gobierno de españa y el gobierno vasco no hacen exigir

de este requisito que colaboren con la justicia para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario de esa forma se les obligaría a colaborar con la justicia

interesante y fundamental para poder esclarecer esos crímenes usted defendería esta medida

nosotros sí lo hemos defendido aquí y nos hemos quedado solos hace una semana

en la primera intervención haciendo alusión al plan de paz y convivencia por lo tanto el gobierno vasco está en acción cumpliendo lo comprometido y cuando usted habla de inacción

se refiere también a la guardia civil se refiere también a la audiencia nacional se refiere a instituciones penitenciarias

mire le reitero que este es el primer informe público de estas características el que ha presentado el gobierno vasco en junio del año pasado le reitero que vamos a cumplir tres objetivos conocer cuántos casos no han sido tratados como corresponde

qué procesos han seguido y clarificar en qué situación se encuentran actualmente queremos clarificar para actuar para exigir medidas a las instancias competentes para garantizar los derechos de verdad justicia y reparación a las víctimas beraz lan isila egin behar da

diez millónes de euros a la real sociedad para la remodelación de anoeta

en un momento de recortes sociales en un momento de recortes en educación de recortes en sanidad cómo puede justificar el gobierno vasco la aportación de diez millónes de euros para esta cuestión en fin me imagino que el gobierno habrá realizado algún tipo de estudio para justificar

dos simples pinceladas la aportación de la real sociedad

teniendo en cuenta solamente el efecto directo ha sido de noventa y ocho millónes de euros esto supone

así mismo el total abonado por el club a las arcas forales en el concepto

ha sido de catorce millónes de euros efectivamente

y sin duda alguna contrastados por este gobierno señor maneiro en segundo lugar

es un hecho que el treinta y uno de enero de dos mil trece el ayuntamiento de donostia aprobó por unanimidad insisto con el apoyo de todos los grupos políticos municipales la renovación del estadio de anoeta eta hirugarrenik

excusas baratas para entregar diez millónes de euros a la real sociedad excusas baratas que nos salen ciertamente caras al conjunto de la ciudadanía ustedes entregan diez millónes de euros sin haber realizado un estudio económico financiero sobre el coste real de las obras y sus efectos

del proyecto nosotros le preguntamos cuál es el estudio que ustedes manejan y ustedes para justificar la entrega de diez millónes de euros a la real sociedad nos entregan

absoluto escándalo el gobierno entrega diez millónes de euros para la remodelación de anoeta catorce millónes de euros para el buesa arena cincuenta millónes de euros

para san mamés todo esto en plena crisis económica sin contar aportaciones

de otros gobiernos en plena crisis económica en pleno recortes sociales y lo que es grabe en este asunto concreto

esta entrega con un estudio realizado por la real sociedad por el propio interesado pero ustedes no han realizado ningún estudio paralelo para que se pueda justificar

realizado por la real sociedad es el cuento de la lechera suma por ejemplo como incrementos en los ingresos los incrementos producidos por los derechos televisivos que puedan alcanzarse en los próximos años cuando no tiene nada que ver con la remodelación del campo de anoeta se realizan cálculos absolutamente ficticios y es absolutamente falso

radicalmente falso son datos ficticios es el cuento de la lechera aparte que numerosos gastos

en relación a la seguridad pública o transporte público

que en fin nos han analizado esta especie de estudio

el cuento de la lechera pero es que es responsabilidad del gobierno hacer un estudio para justificar la aportación de diez millónes de euros según el resumen de este estudio la remodelación de anoeta supone

trece millónes de nuevos ingresos y solo seis coma cuatro de nuevos gastos es decir habrá un beneficio anual de seis coma cinco millónes de euros para la real social conclusión

pero si gracias a la aportación del gobierno de diez millónes de euros en los próximos años va a tener un beneficio de seis coma cinco millónes de euros anuales la conclusión es que se lo paguen ellos cómo vamos a pagar los ciudadanos diez millónes de euros para un campo de fútbol

guri etorriko dira nolabait eta azkenean hori da guk egin nahi duguna en todo caso cabe recordar que la concesión de subvenciones públicas

está perfectamente regulada en la ley del deporte del país vasco eta horrela guk

se han ido produciendo por parte del portavoz del gobierno una serie de declaraciones que a nosotros nos preocupan mucho por su contenido porque el portavoz del gobierno más allá de ser el portavoz de un gobierno

que hace una opinión de lo que pasa en este país y nos ha parecido especialmente grave y en cierto modo lamentable que por ejemplo alguien que se ha comprometido con un acuerdo

que este es el acuerdo sobre la ley municipal salga a decir que se va a incumplir nos ha parecido grave que se hable

cuando no hay ningún elemento o ningún fundamento que pueda acompañar esa aseveración nos ha parecido especialmente grave que como consejero diga que le preocupa que tubacex se vaya del país vasco pero que como consejero de itzarri pues puede estar hasta contento porque si le va bien pueden llegar recursos para

o de la que forma parte también nos ha planteado recientemente que ante los actos vandálicos que se produjeron en bilbao con ocasión de la cumbre económica

la mejor pruebade ello es que bilbao no había ardido en llamas ante

afirmaciones ante estas declaraciones como portavoz de su gobierno que afectan que incumben al país vasco a la imagen de este país a lo que aquí se plantea políticamente yo creo que merece la pena una valoración por su parte

realiza para dar cuenta de las decisiones y explicar también a la sociedad la posición del gobierno sobre las más diversas materias y valoró declaraciones realizadas

las valoró en su contexto y no como usted hace fuera de contexto valoro por lo tanto la labor o la labor del portavoz del gobierno señor erkoreka quien cuenta con todo mi reconocimiento

lehendakari no sé por qué esperaba de usted una respuesta de carácter corporativo

ante cosas que producen un cierto esperpento un cierto sarcasmo y que precisamente esta parte frívola de ese esperpento y ese sarcasmo es muy desagradable para quienes tenemos una responsabilidad institucional mire que su portavoz

incumplimientos que su portavoz banalice el vandalismo que su portavoz especule con eta y que cree alarma que

exprese que es que no le entendemos en los contextos como si gracias a esa palabra mágica del contexto uno pudiera decir lo que le diera la gana y además como

que efectivamente es una expresión de carácter absolutamente personal e intima

el portavoz puede decir lo que le venga en gana y puede incluso hacer un esperpento de este país en algunas de las cosas mire usted va

deusto y predica prudencia autocontrol

usted cree que estas declaraciones significan prudencia significan autocontrol

al miedo que han sufrido los ciudadanos en bilbao cuando la cumbre económica y los actos vandálicos se puede hacer unas declaraciones tan frívolas como esa oiga usted

con eta se puede frivolizar de esta forma con las escisiones en eta

se pueden hacer estas risas con el asunto de tubacex oiga usted se cree que cuando para que él sea portavoz y usted lehendakari necesita unos apoyos y un gobierno

resulta que esos acuerdos dice que los va a incumplir antes incluso

en funcionamiento oiga usted por la estima por el aprecio que tiene por el cariño y por el contexto es capaz de avalar todas estas barbaridades pues si usted sí yo no y si quiere hacer pinitos de incontinencia verbal yo le aconsejo
una temporada al club de la comedia eskerrik asko prieto jauna erantzuteko

en su última intervención y en su última frase le he reconocido en su estilo genuino en todo caso conozco

conozco sus juicios de valor sobre lo qué es la labor del portavoz del gobierno vasco y en modo alguno creo que son comparables con algunos hechos

le voy a hablar de hechos memorables hechos y no palabras hechos y no palabras que la sociedad vasca ha conocido cuando ustedes hablan de la ley municipal

el hecho es que no lo hicieron cuando ustedes hablan de eta cuando ustedes hablan de eta

a una mesa con eta y ahora sin embargo el hecho que no aceptan sentarse en una ponencia de paz y convivencia

cuando ustedes hablan de tubacex la sociedad recuerda que su partido ha apoyado recursos contra el concierto económico promovidos por gobiernos limítrofes cuando hablan de pensiones

cuando ustedes hablan de la cumbre económica la sociedad vasca recuerda que un destacado miembro de su partido era uno de los ponentes

el único partido que participó dentro y protestó fuera un hecho difícil de entender la sociedad vasca tiene una opinión muy bien formada durante estos años sabe que a nosotros nos va a encontrar en la defensa de los intereses de euskadi ustedes pueden decir hoy que defenderán lo que decida el parlamento de cataluña

decir hoy que presentará una moción de censura en navarra y mañana hacer lo contrario decir hoy que jamás pactarán con el partido popular y mañana volver a hacer lo contrario señor prieto este gobierno habla claro y actúa con coherencia eso sí se lo reconozco no contamos con el don de la infalibilidad como usted eskerrik asko

gracias presidenta desde el escaño con su permiso

si considera que el tribunal vasco de cuentas públicas está politizado

qué medidas el gobierno vasco estaría dispuesto a apoyar o cuáles medidas consideraría el gobierno vasco que pudieran ser positivas para avanzar en la despolitización del tribunal vasco de cuentas públicas es decir si existe el problema y en caso de que exista este problema

considera que podríamos tomar quizás entre todos gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

quizás habría que buscar la fórmula para que los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas no fueran elegidos por los partidos políticos porque esto incide después en el trabajo que realizar este tribunal vasco de cuentas públicas a la hora de analizar determinados

si los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas son elegidos por los partidos políticos puede ocurrir

que lo que hagan estos miembros del tribunal sea servir a los intereses de esos partidos políticos que

usted dice que este organismo es muy importante yo creo que lo importante sería que tuviéramos

que no estuviera politizado que no estuviera dividido en cuotas partidarias lo importante sería tener un tribunal que ejerciera perfectamente su labor de control económico financiera de todos aquellos entes o gobiernos o presupuestos que tuviera que analizar y es

esta politización que siempre ha existido lo cierto es que ha habido varios informes en los últimos tiempos que han sido limitados que han sido castrados han sido rechazados los informes preparados por el ponente para beneficiar los intereses de determinados partidos políticos me refiero en concreto a un informe relativo a lanbide y un informe relativo a aic para beneficiar en este caso los intereses del partido nacionalista vasco y del partido socialista

podríamos asistir o estar asistiendo a una especie de pacto entre el partido nacionalista vasco y el partidos socialista de euskadi para taparse sus vergüenzas ya digo en los últimos tiempos pues ha ocurrido que el propio

ha enviado una carta a los diferentes grupos parlamentarios avisando que determinados informes que se puedan producir en el futuro se van a aprobar va a haber votos en contra y se van a retrasar esto es un hecho insólito nunca había ocurrido y por lo tanto nuestra obligación es atender este grave problema despolitizar en lo que podamos el tribunal vasco de cuentas públicas que realice perfectamente

y que no sirva ninguno de sus miembros a ningún interés de ningún partido político creo que habría que buscar la fórmula para despolitizar

vasco de cuentas públicas puede ocurrir en los próximos meses en relación por ejemplo a epsilon puede ocurrir que hubiera un pacto una especie de pacto entre

reducir el informe que pudiera relájense ustedes no se pongan nerviosos relájense y no se pongan nerviosos podría haber un pacto para reducir

politizan los órganos de la justicia politizan las cajas de ahorros politizan el tribunal vasco de cuentas públicas
y luego gritan eskerrik asko maneiro jauna eskerrik asko maneiro jauna un mínimo de respeto

la expresión de la democracia es la legitimación popular expresada en la diferencia política existente en grupos parlamentarios la pluralidad política es una

actuación en representación del parlamento los trabajos previamente a su asignación tienen que ser consultados por el parlamento los que hay que hacerlos anualmente y le voy a decir una cosa más los miembros del tribunal de cuentas tienen a efectos de incompatibilidades de

prohibiciones limitaciones las mismas que tiene la judicatura el poder judicial están asimilados

en el ejercicio de esa función de fiscalización de la gestión económico financiera de las cuentas públicas de todo el sector público lo cual tiene una enorme trascendencia están

remover salvo que hubiera una flagrante infracción del ordenamiento y le voy a decir una cosa más

tiene que tener una mayoría cualificada tiene que haber mayoría absoluta esa es la mayor expresión de la democracia organismo institucional dependiente del parlamento organismo institucional

de fiscalización en delegación del parlamento el parlamento es soberano para regular el tribunal de cuentas y por lo tanto

que haga usted posible que un parlamentario pueda expresarse desde la tribuna sin que sea
mandado a callar por otros grupos parlamentarios bale entzun dut eseri zaitez bale nahikoa da libertad de expresión y capacidad de preguntar sin que nadie me insulte maneiro jauna

eta lana jarriko genuela martxan por tanto es público y notorio nuestra postura lo ha sido y lo sigue siendo sin olvidar además que existiendo en la actualidad un parque de generación eléctrica moderno seguro y competitivo

no creemos necesaria ni por eficiencia ni por garantía de suministro ni por calidad la línea de actuación que ponga en marcha la energía nuclear

no existe energía nuclear en el mismo además quisiera concluir reiterando nuestra firmeza en esa postura que hemos venido manteniendo y por este motivo

acordado en este parlamento en la proposición no de ley aprobada el pasado seis de febrero y en coherencia con la opinión que siempre hemos venido manteniendo como gobierno

económico y competitividad que dirijo nos hemos puesto en contacto con los consejeros delegados tanto de iberdrola como de endesa que son los accionistas principales

de la central y posteriormente también con nuclenor con la pretensión que con anterioridad a la toma de cualquier decisión

de actividad tengan en cuenta nuestra postura contraria como gobierno como grupo parlamentario y

actúa contra los intereses de la ciudadanía el gobierno vasco va a actuar contra los interese económicos de esa empresa y no es por un capricho

es porque se pone en riesgo la seguridad y la salud de muchísimas personas es porque se permite

o porque se quiere solo pensando en intereses economicistas solo pensando en el interés privado de unas empresas seguir con una amenaza nuclear a las puertas de álava a las puertas de euskal herria es por eso por lo que se pregunta

se deberían cuando menos revisar o analizar teniendo en cuenta

cuál es la intención de esa empresa si decide abrir garoña otra vez

otras cuestiones pero en este caso es porque van a poner en riesgo la seguridad de muchísimas personas y es en definitiva el interés público
lo que creemos que el gobierno vasco debe salvaguardar eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

clara nuestra postura evidentemente también es clara nuestra postura en otros ámbitos

también pasa porque las redes eléctricas se renueven porque nuestras empresas eléctricas que renuevan esa redes tengan empleo y den empleo a muchas de las personas que vivimos aquí porque desarrollemos las energías renovables

redes eléctricas inteligentes sigan trabajando luego

en contra de la energía nuclear sí evidentemente pero con el trabajo de una compañía eléctrica que también garantiza otros aspectos importantes para nuestra sociedad evidentemente trabajaremos colaboraremos y seguiremos impulsando actuaciones que son importantes para todas las personas que viven y trabajan en euskadi

pero a favor de otras también porque son importantes para este país eskerrik asko

lehendakari jauna ubera andrea y agradecer el cambio de orden a sus señorías

me gustaría comenzar dejando claro en esta cámara que el transporte sanitario en euskadi siempre

de esta legislatura es decir el departamento de salud no ha tomado ninguna medida excepcional a este respecto en los últimos meses me parece también importante

de que la actual situación de huelga de ambulancias es consecuencia de esta externalización o de la falta de seguimiento del servicio por parte del departamento de salud y sinceramente señorías nada más lejos de la realidad y quiero dejarlo claro esto no es así

comparto con usted la opinión de que cuando se externaliza la gestión de un servicio es obligación y responsabilidad de la administración realizar labores de seguimiento y control

garantizar que se cumplen los requisitos recogidos en la contratación y garantizar así mismo que se respeta la dignidad de los trabajadores y

de verdad señora ubera no podemos estar más de acuerdo porque es precisamente lo que estamos haciendo y venimos haciendo desde que llegamos al gobierno el departamento de salud

en todo el proceso que engloba a la red del transporte sanitario tanto en los concursos públicos como en sus adjudicaciones y por supuesto en la verificación del cumplimiento de las condiciones recogidas en los pliegos por parte de las empresas proveedoras de estos servicios sanitarios

programado son las delegaciones territoriales las que han venido manteniendo de forma descentralizada

como en el programado con independencia de que también hemos actuado

de contratación sanitaria del departamento de salud por otra parte hay que recordar que el departamento venía manteniendo contratos negociados con la dya y la cruz roja

tiene usted razón hay una diversidad de empresas proveedoras cada una de ellas con convenios diferentes y esto ha configurado un escenario complejo desde todos los puntos de vista

en lo que se refiere a las condiciones laborales muy diferentes de unas empresas a otras pero permítame y creo que usted lo sabe no soy responsable de la secuencia de dispersión estamos tratando de arreglarla siguiendo con el repaso de la situación hay que señalar que en este escenario se modifica además de forma sustancial

al departamento entonces de sanidad a sacar a concurso la prestación sanitaria de la

que previamente no había salido este concurso se licitó al precio que el departamento venía pagando a estas organizaciones de servicios

que por las características de las entidades sin ánimo de lucro este coste era notablemente inferior al que suponía esta actividad

del sector del transporte sanitario y esto es una de las conclusiones de por qué el mismo servicio tiene esta dispersión y tiene precios

se procedió a licitar un segundo concurso el precio de licitación y lo tiene usted en el boletín era suficiente para mantener las condiciones laborales

porque el precio de licitación es lo que el departamento está dispuesto a pagar por el servicio pero el precio de adjudicación es la oferta por el que las empresas

estaban dispuestas a prestar el servicio dentro del margen de la ley que permite la ley de contratación de las administraciones públicas

las empresas licitadoras presentaron bajadas significativas en las ofertas pero dentro del marco legal de la contratación pública esto

ley tres barra dos mil doce de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral ha generado la actual situación y el escenario que tenemos dicho esto

que cumplimos con nuestra obligación y responsabilidad política de realizar labores de seguimiento y control horregatik

que todas las deficiencias que se han detectado se engloban en la categoría de simples irregularidades sin trascendencia directa para la salud de las personas atendidas ni perjuicio económico para la administración ni la calidad del servicio de transporte urgente sanitario

y a la atención sanitaria se están viendo afectados en ningún momento respecto al segundo concurso que inició su actividad el catorce de enero de este año el departamento de salud

del contrato de la red de transporte sanitario urgente llevamos a cabo una primera inspección a todas las bases y a todas las ambulancias

contrato que empezó a prestar actividad en el mes de julio inspeccionamos

durante el mes de agosto del año pasado en concreto las inspecciones se realizaron los días cinco seis siete nueve doce trece catorce y dieciséis de agosto es decir al mes siguiente de la puesta en funcionamiento de la adjudicación de las inspecciones se levantaron actas y la conclusión general que se obtuvo es que todas las ambulancias inspeccionadas cumplían los requisitos establecidos en el pliego de condiciones técnicas

y que se detectaban algunas carencias de orden menor el trece de septiembre se notificó a las tres empresas adjudicatarias las deficiencias detectadas

subsanadas se realizó una segunda inspección en octubre del dos mil trece reiterando la obligatoriedad

junto al anuncio de un expediente de imposición de penalidades la tercera inspección a las bases

que presentaban deficiencias se realizó en noviembre del dos mil trece respecto al segundo concurso que empezó el catorce de enero de dos mil catorce un mes después de iniciada la actividad el diecinueve de febrero

de este nuevo contrato y el buen funcionamiento del servicio de transporte sanitario urgente

catorce lotes de los cuales forman parte cuarenta y dos ambulancias se prevé que dichas inspecciones finalicen a lo largo de las próximas semanas como me imagino que sabrá

se ha entrevistado con representantes de los trabajadores y también de las empresas

y de la valoración que hacen de sus condiciones y ambiente laboral así el cuatro de diciembre del año pasado nos reunimos con comisiones obreras el veintisiete de noviembre

el nueve de diciembre con ambulancias bilbao el pasado siete de febrero

también el trece el dieciocho y el veinticinco de este mismo mes posteriormente

y conversaciones telefónicas muy frecuentes durante el presente mes de marzo para llegar a una solución de la situación actual

negociación colectiva nuestras posibilidades más allá de los intentos de diálogo que de forma permanente estamos generando son limitadas

la titularidad de las relaciones laborales son de exclusiva responsabilidad de la contratista y le leo textualmente quedando obligada a cumplir respecto de su personal los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empresario

y el resto de las disposiciones vigentes tanto en materia laboral como en la referida

vigilantes en el cumplimiento de esta disposición y por supuesto de todos aquellos términos que sean de nuestra competencia y que tengan incidencia en la calidad de las condiciones laborables

y esperamos una pronta resolución del conflicto el aspecto de la calidad del servicio creemos que está

ubera andrea disculpe que apunte para no olvidarme de lo que me refleja

quiero aclarar porque usted lo sabe que no se está aplicando la reforma laboral y no se está aplicando porque nos hemos ocupado bastante de que no se aplique la reforma laboral

es total en el transporte sanitario urgente supone un coste en salarios menor del cuarenta por ciento sobre lo que hay

bastante bastante de que no se aplique segundo la fragmentación existente

no ayuda en nada a la gestión actual pero discúlpeme no tengo ninguna responsabilidad en la fragmentación que existe

adieraziko dizkizuet me gustaría referirme a los pasos que tenemos previsto dar estamos convencidos y estamos detrás

y de las empresas y de los trabajadores para que el conflicto se solucione y esperamos por los ciudadanos por los trabajadores que se solucione

además el departamento de salud tiene previsto licitar de nuevo las bases correspondientes al primer contrato cuya adjudicación será

la adjudicataria que reciba pueda abordar la gestión de los recursos y los acuerdos laborales que surjan de la mediación si es que se producen en este sector a partir de ahí cuando finalice el contrato actual de las empresas que han sido adjudicatarias del segundo contrato intentaremos unificar toda la

con un precio de licitación que permita mantener las condiciones laborales de los trabajadores por otro lado siempre hemos sacado los concursos sabiendo cuáles eran las condiciones laborales de los trabajadores y nunca se han sacado ni ahora

por un precio que no pudiera mantenerlos así mismo me gustaría también hacer un par de puntualizaciones cuando señala que se están precarizando las condiciones laborales en el sector quisiera volver a dejar claro que hablamos de trabajadores de empresas privadas obligadas también a respetar sus acuerdos laborales con las empresas y a la autoridad laboral y a responder ante la misma en caso contrario si efectivamente

por los que este conflicto debe discurrir para solucionarse lehen ere esan dizut enpresa pribatuen eta bere langileen arteko

egiten ari gara baina guk ere gure mugak ditugu por otra parte me ha parecido entenderle que cuestionaba la calidad del servicio del transporte sanitario es fácil cuestionar abiertamente sin ofrecer ningún dato bien yo se los voy a dar en estos ocho meses últimos que han estado en funcionamiento los nuevos proveedores de la rtsu los ciudadanos han presentado ocho reclamaciones

servicios prestados es decir no ha llegado ni a una reclamación

es un dato que refleja la conformidad de los ciudadanos con el servicio del transporte sanitario

la calidad del servicio para los ciudadanos del malestar de los trabajadores que sí han visto

nosotros tenemos compromiso con las personas tenemos compromiso con los ciudadanos y también con los trabajadores pero hay situaciones que tiene una gestión

y estamos en la solución eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

quiero empezar esta intervención dirigiéndome a todos los parlamentarios y al señor lehendakari

en esta intervención de control parlamentario del área de la salud en el reconocimiento de uno de los arquitectos de la sanidad pública vasca fue el primer director

posteriormente cogió el testigo de un sistema público incipiente cuyos cimientos

lo que se conformó en un modelo nuevo moderno y para todos iñaki azkuna fue el gran constructor

así se ha ido construyendo el principal proyecto compartido por todos los ciudadanos vascos el que hasta el día de hoy incluso desde la diferencia política nadie cuestiona y es el que hace posible que cada persona con independencia de su ideología

pueda ejercer plenamente su derecho a la salud y en estos tiempo en los que quienes se ven obligados a reclamar hay gente que se ve obligada reclamar desde la calle

es necesario reconocer lo que iñaki azkuna contribuyó a construir e impulsar el reconocimiento de hoy además es para transmitir nuestro reconocimiento y afecto a su familia personal y política hoy representada aquí por el señor lehendakari

reafirmar nuestro compromiso activo para seguir mejorando corrigiendo errores y ampliando derechos compromiso que continua desde la acción de oposición en este parlamento con iniciativas y con el control de la acción al gobierno señor consejero hace un mes hoy le preguntábamos por el posible cambio de criterio con respecto a las listas de sustituciones derivadas de la ope

el consejero negó tal cambio aunque dedicó el grueso de su intervención a desacreditar

algo bastante habitual pero es cierto que con poca convicción por nuestra parte ratificó que no había cambio de tal criterio

priorizará los aprobados de la última ope a renglón seguido

desgranó exclusivamente los méritos y los datos de quienes tenían experiencia pero habían suspendido defensa no necesaria

se ha intentado desmerecer los méritos y capacidades de las personas que han suspendido como al parecer se derivaba de aquella intervención y como al parecer ha entendido alguno de los afectados que de forma anónima

al contrario desde nuestro grupo valoramos la experiencia que se adquiere mediante el trabajo pero el sistema

es con una fase eliminatoria sobre un temario propuesto un examen

se valoran los méritos que pueda aportar para nuestro grupo el mérito principal en la fase de concurso

y la experiencia acreditada pero todo ello no nos hace olvidar que efectivamente

que a pesar de su experiencia no aprobaron el examen por eso hemos querido escucharlos

en el parlamento que comparecieron en comisión de salud y consumo por cierto esta misma parlamentaria les acompañó al registro en el que solicitaron la comparecencia una vez oídas sus explicaciones y habiendo atendido también hace diez días en comparecencia quienes aprobaron la ope nos ha parecido interesar que nos ratifique su opinión el consejero y queremos conocerla porque este colectivo el de los suspendidos nos dijo en comparecencia y nos lo aportó en testimonio escrito dijo exactamente

en mantener la lista única esta documentación y estas explicaciones

y que priorizará a los aprobados pero como los suspendidos dicen otra cosa

alguna cosa algún acuerdo alguna conversación al colectivo de suspendidos que haya podido entender esto el colectivo de suspendidos además solicita

respecto a preguntas que quieren impugnar incluso quieren impugnar la base de la convocatoria en fin tienen un montón de reivindicaciones por nuestra parte habiendo escuchadolos a todos seguimos pensando que el criterio

en mayo de dos mil once es más acorde con los criterios de acceso a la función pública examen eliminatoria con temarios generales sin preguntas

por la valoración de la experiencia la formación y el euskera pero sobre todo creemos que no se deben cambiar las reglas porque es lo que garantiza la seguridad jurídica

que esperemos puedan producirse para reducir la interinidad y garantizar la estabilidad de los trabajadores

el saber si el consejero ha podido llegar a algún acuerdo con el colectivo de suspendidos

egun on berriro lo primero agradecerle las palabras

don iñaki azkuna al que estoy seguro de que todos opinamos lo mismo y de verdad agradecérselo de todo corazón en segundo lugar y sin que pase más

tiene usted todo mi afecto nunca he intentado desacreditarla créalo de verdad y además yo soy de los que está convencido de que por la talla de sus rivales le conocerán

alegia beti ere mahaia sektorialean nuestras intenciones siguen siendo las mismas que he manifestado en la comparecencia que ya tuvimos buscar soluciones justas

equitativas y factibles para todo el colectivo de trabajadores que como en el caso de las personas que opositaron en dos mil once lo único que pretenden es ejercer su derecho a acceder a un puesto de trabajo

una cosa más digna soluciones que como hemos defendido siempre entendemos que deben darse en el marco de la mesa sectorial buscando el mayor consenso social y sindical posible porque hablamos de contratación temporal en la administración pública

ha estado dentro de nuestros planteamientos cambiar de forma unilateral el actual sistema de contratación temporal como usted sabe

llevar una propuesta a la mesa sectorial no hemos hecho otra cosa balizko edozein aldaketak sindikatuen babesa

de este procedimiento si la hubiere deberá contar de antemano con un respaldo sindical en el seno de la mesa sectorial de salud si no no se va a modificar porque repito siempre hemos entendido que la contratación es un aspecto

siempre ha sido así y yo estoy seguro que el acuerdo del consejo de administración del año dos mil once aunque no contó con el apoyo de ningún sindicato me consta

tampoco le digo nada nuevo cuando afirmo que en ningún caso en ninguno vamos a favorecer medida alguna que suscite o alimente el enfrentamiento entre colectivos de personas sin trabajo estable no lo hemos hecho antes no es nuestro estilo es lo que menos nos gusta de toda esta situación y no lo vamos a hacer ahora

y que no han conseguido plaza nos merecen todo el respeto del mundo los que han conseguido plaza

y los suspendidos estamos convencidos de que la gestión de la contratación temporal máxime en estos tiempos de escasez de trabajo y tratándose de empleo público

y tratar de buscar un equilibrio razonable entre los conocimientos

también como he expresado con anterioridad y usted lo conoce nos parece un hecho extraordinario de difícil justificación que seis de cada diez personas

de esa segunda lista que ha día de hoy es el escenario vigente y van a tener pocas posibilidades de acceder a un trabajo en el sistema vasco de salud

porque es obvio que no todas las personas pueden obtener una plaza

pero de ahí a que más del sesenta por ciento de las personas que se presentaron en el conjunto de las categorías con formación reglada y experiencia no consigan

pues qué quiere que le diga yo no lo acabo de ver absolutamente correcto y seguramente no es responsabilidad del anterior consejero

lo que no quita es que la responsabilidad continúa siendo de quien convoca la ope estoy hablando por ponerle un ejemplo

que se presentaron suspendieron son enfermeras a las que la universidad

asignaturas de su diplomatura y nosotros en la administración después de años de experiencia en un examen de conocimientos teóricos

les suspendemos les ponemos menos de cinco sobre diez yo realmente y estoy seguro que usted lo comparte conmigo pues creo que algún problema debió haber

me pregunta usted con reiteración que qué voy a hacer lo volveré a decir lo expresado con anterioridad este departamento de salud

en mayo del dos mil once por el que el anterior gobierno modificó el criterio de contratación temporal que por otro lado regía desde mil novecientos noventa y ocho y tampoco había generado problemas

le invito a que viendo que como creo que ve el problema que se está generando no intentemos quedar bien con todos cosa que va a ser difícil e intentemos

y ayudar para buscar una solución la mejor para todos konponbideak bilatzeko garaia dugu arduraz jokatuta al menos vamos a intentar obrar con responsabilidad evitando la tentación de avivar conflictos que enfrenten a personas

y pensando sobre todo en que quienes aprueban y quienes suspenden son personas trabajadores que han invertido parte de su vida y su esfuerzo

algo que todos desearíamos estas coordenadas son las que sinceramente

unos y otros es en las que espero que este gobierno y los grupos políticos de esta cámara podamos encontrarnos para esto al departamento de salud y a osakidetza nos tienen a su disposición

que inician un nuevo camino una nueva amistad en segundo lugar le digo que

evidentemente pero discrepo en alguna mire usted yo creo que cuando una administración saca una ope no

porque no se busca el reconocimiento mediante la aprobación de un examen a quienes se presentan

y ya están preparados para entrar en la administración sin embargo la administración exige una selección

vamos a decir los que demuestran mayor número de conocimientos mediante la aprobación de un examen y usted sabe muy bien que hay administraciones en las que la fase de

varias fases todas ellas eliminatorias y quien no llega a la final pues no cuenta

tampoco para la lista de contratación entonces cuál es el problema en este caso en este caso como usted mismo ha señalado es la escasez de trabajo siempre va a haber enfrentamiento cuando hay poco trabajo para contratar pero

dejar las cosas claras cuáles son los criterios tanto para entrar a un trabajo fijo como a una de una lista de sustituciones que se pueden hacer otras

ya lo sabemos pero el principio de seguridad jurídica hace que mientras se han aprobado unas normas

sabiendo que se está preparando para una posible plaza o para una posible sustitución no se puede ahora cambiar los criterios porque los ciudadanos no lo entenderían tienen que tener unas relaciones claras de cuáles son sus derechos y sus relaciones con la administración

en que no cabe la modificación de los criterios naturalmente que después de la siguiente ope cuando se pueda celebrar se pueden cambiar los criterios y los opositores si conocen de antemano cuáles son los criterios para hacer el examen y cuáles son los criterios

ni ellos ponen los criterios ni los pueden modificar pero sí quieren conocerlos para poder respetarlos como décimos el problema sigue siendo

y la administración evidentemente no puede poner trabajo para todos pero sí puede y debe hacer el esfuerzo para intentar que este trabajo aunque sea temporal sea el máximo que se pueda ofertar en estos momentos a la población

analizar la ope por lo tanto no me voy a reiterar simplemente manifestarle

habitualmente hay más candidatos que plazas

ahora entre no darles la plaza y suspender mayoritariamente

hay una pequeña diferencia a veces la forma

cuenta y se lo voy a reconocer yo he estado en la administración y hemos hecho muchas ope no creo que esto sea responsabilidad del consejero anterior

tribunales pero sí es verdad que es responsabilidad del departamento velar por la homogeneidad de los exámenes en los tribunales para intentar velar porque el resultado sea adjudicar al mejor preparado y al que más se la merece y por lo menos no agravar la moral

su acceso al trabajo temporal no me voy a reiterar ya lo he dicho no vamos a cambiar el anterior

hay un acuerdo en la mesa sectorial pero también permítame usted ya le he dicho que no lo vamos a cambiar el acuerdo

fue un acuerdo que cambió lícitamente acuerdos previos por lo tanto

no lo vamos a cambiar porque no entendemos entendemos que es negociación colectiva pero denme también el que para cambiar un acuerdo de un consejo de administración hay otro acuerdo del consejo de administración

no estaba en las bases de la ope ya lo dijimos la vez anterior y luego

nosotros somos la administración que tanto en la época en la que ha sido gobernada por ustedes la del departamento entonces de sanidad

que somos el único sistema sanitario de todo el estado que ha sacado una ope por legislatura esto es así ahora bien

ha habido más de tres personas por plaza en la mayor parte de las categorías esto no es nuevo siempre ha habido por lo tanto

y debemos ser mucho más cuidadosos ahora no achaquemos el número de personas que se presentan a la ope a la crisis y a la escasez de empleo porque esto ha sido una constante

en euskadi la administración pública hemos sido en el sistema sanitario muy atractivos y además hay muchas categorías profesionales que prácticamente solo pueden trabajar por nuestra propia configuración del sistema sanitario en

yo voy a insistir y tiene usted mi mano tendida para nosotros lo importante es buscar

y creo que estamos a tiempo soluciones justas razonables equitativas y factibles con responsabilidad si puede ser desde el mayor consenso político social con ellos

y sindical en el marco que corresponde que seguimos insistiendo que es la mesa sectorial de salud sin provocar más daño que el que se quiera reparar y hay daño vamos a no insistir en él recordando que la gestión de la contratación temporal

y requiere equilibrio y mesuras para nosotros estas son las claves responsabilidad equidad y si fuera posible consenso

darpón jauna en el pleno del parlamento vasco en sesión celebrado el catorce de noviembre de dos mil trece se rechazó toda práctica económica y financiera abusiva

a que procedan de oficio a eliminar en sus contratos hipotecarios las cláusulas abusivas especialmente las denominadas cláusulas suelo y abstenerse a utilizarlas en lo sucesivo en sus contratos de prestamos hipotecario con consumidores y usuarios

que denuncien las cláusulas abusivas de las entidades financieras todos los medios y la protección legal de la que dispone kontsumobide

de inspección a las entidades de crédito que operen en la comunidad autónoma vasca para detectar y sancionar el uso de las cláusulas abusivas así como a remitir a esta cámara en el plazo de tres meses los resultados de dicho plan transcurrido ya ese plazo le preguntamos si se ha elaborado desde el departamento de salud y consumo el plan integral de inspección a las entidades de créditos que operan en la comunidad

una pequeña puntualización desde el departamento de salud y consumo no sé lo que estarán haciendo desde el departamento de salud que es

el parlamento aprobó una enmienda transaccional para elaborar y ejecutar un plan integral de inspección a las entidades de crédito que operan en la comunidad autónoma y para detectar y sancionar el uso de cláusulas abusivas dado el plazo del tiempo transcurrido

está trabajando en ello aún no ha concluido este plan integral de inspección igarotako denbora igarota nahiz eta

a pesar de que desde esta cámara se consideró el carácter de urgencia

en el calendario de campañas es una tarea que necesita algo de tiempo a pesar de ello se está dando un tratamiento lo más rápido posible para acorde a la realidad del propio instituto y de las posibilidades de su carga de trabajo se ejecute así

está trabajando en él pero de momento no ha concluido el trabajo emprendido eskerrik asko

señor consejero hace dos días el gobierno presentó en la comisión de instituciones e interior el informe del grado de cumplimiento de las iniciativas parlamentarias correspondientes al año dos mil trece y en lo relativo a la proposición no de ley sobre las cláusulas abusivas de los bancos

se había puesto en marcha una campaña de inspección a entidades financieras

este informe ha sido presentado en el parlamento días después de haber registrado el grupo socialistas vascos la pregunta oral que hoy se sustancia en este pleno pero no responde para nada

se trata de detectar y sancionar el uso de cláusulas abusivas jueces por la democracia dentro de las conclusiones aprobadas

instaba a los ejecutivos de las comunidades autónomas a controlar mediante inspecciones preventivas las prácticas de las entidades financieras y a sancionar a aquellas que incurra reiteradamente en el uso de cláusulas abusivas ante esta situación es imprescindible que el departamento de salud y consumo que añado yo asuma el liderazgo de la detección y sanción del uso

por ahí kontsumobide es competente y tiene capacidad para imponer sanciones debe y tiene obligación de defender a los derechos de los consumidores y usuarios atendiendo a su ley fundacional de la mejor manera posible la ley de consumidores y usuarios es de aplicación en los contratos de prestamo y recoge las sanciones que serán impuestas en caso de incumplimiento

de un cliente de eliminar la cláusula suelo pero le resultará más difícil ignorar las sanciones económicas que se les imponga a través de kontsumobide

ya que si el banco reclama contra la sanción impuesta lo hará contra la resolución de kontsumobide no contra la persona

la que pleitee en su nombre a este respecto no debemos olvidar señor consejero que ya existe una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de vitoria gasteiz

de consumo a la caja rural de navarra por incluir cláusulas abusivas en un prestamo hipotecario por lo tanto entendemos que ante una reclamación sobre el uso de cláusula suela no atendida por la entidad

rápidamente kontsumobide tiene la obligación de inspeccionar

hipotecarios y tiene la obligación de proteger a los consumidores y usuarios afectados

el gobierno realizó los departamentos y puso los nombres oficiales que él entendió que eran los adecuados le relataré

en qué estamos trabajando en kontsumobide respecto a lo que usted me ha solicitado de modo coordinado entre la unidad de reclamaciones

así como la unidad de inspección y control de mercados de kontsumobide se ha analizado

el abordaje del plan de inspección requerido por el parlamento vasco y se estableció un plan de trabajo y un cronograma el catorce de enero se realizó un requerimiento de información a todas las entidades financieras al objeto de recaudar datos que permitieran conocer la situación

por cada una de las mismas una vez analizada la documentación aportada por las entidades y la no respuesta o respuestas incompletas de algunas de ellas el pasado veinticuatro de febrero

ha sido preciso realizar un nuevo requerimiento de información complementaria a todas las entidades financieras desde comienzos de esta misma semana estamos manteniendo reuniones bilaterales

al objeto de contrastar la información obtenida así como de cara a conocer su actuación en materia de cláusulas de suelo en contratos de prestamo hipotecario a futuro está previsto la realización a finales del mes de marzo semana que viene de una campaña de inspección presencial

en todas las entidades financieras que operan en la comunidad del análisis de las informaciones y datos recogidos se elaborará el informe que será remitido

tal que como se solicitó y de esto se derivarán las acciones de información prevención y recomendaciones para las personas consumidores y usuarias como acostumbramos a realizar desde kontsumobide si fuera preciso se incoaran los expedientes sancionadores ikus